eta da tax rulings errealitatean

que los enemigos de nuestro sistema de bienestar los enemigos de nuestro modo de vida no están en montañas lejanas ni en desiertos remotos lls que ponen en peligro

nuestros servicios públicos nuestra educación nuestra sanidad nuestras prestaciones sociales

que se llevan sus fortunas que no pagan impuestos que impiden que haya unas normas tributarias

no están en desiertos remotos sino que están entre nosotros con corbata tampoco tienen la piel oscura ni vienen del magreb son otros los que desarrollan los que realizan un fraude masivo un fraude que deteriora la calidad de vida los servicios y los derechos de la ciudadanía

en otros tiempos cuando alguna provincia díscola osaba a contradecir los dictados del imperio

apuntaba los cañones al palacio gubernamental y decían

en estos momentos son los mercados los que apuntan con sus cañones económicos a los pueblos que quieren decidir su destino al margen de su dictadura amenazando

con la incapacidad de acceder al crédito con el hundimiento de las bolsas o de las monedas es una forma modernizada y sofisticada de dictadura y esto lo gestionan

acumuladas entre otras razones gracias al fraude y a la elusión fiscal aberatsentzat ez dago krisirik ez dago krisirik

hay una expresión castellana que refleja muy a las claras lo que está pasando en estos momentos en eso que llaman unos crisis y otros llamamos fraude es una expresión

en esta cámara pero en realidad están miccionando

y nos dicen que llueve los más ricos son cada vez más ricos en el período que para la mayoría de la población ha sido económicamente más duro los más ricos se han hecho más ricos esto no es demagogia esto son los datos

han duplicado su riqueza entre el año dos mil nueve y dos mil catorce en el año dos mil trece hacía falta

a los ochenta y cinco más ricos del mundo para acumular fortunas suficientes o equivalentes al dinero que poseía la mitad de la población del planeta ochenta y cinco personas tenían tanto dinero como tres mil quinientos millónes de personas ahora un año después

como sigamos así vamos a llegar a un punto de concentración absoluta esaten dute

gomendioen artean esaten du hay que distribuir el esfuerzo fiscal de forma justa y equitativa trasladando la carga tributaria del trabajo y el consumo

y el capital la carga fiscal al patrimonio y al capital y de esto nos suena en este país porque tenemos un cierto debate al respecto en el que hay posiciones encontradas

esaten dute besteak beste joaquín arriola profesor de economía aplicada de la upv esaten du una política fiscal expansiva en estos momentos

o con más endeudamiento o con más impuestos sobre el patrimonio y el capital financiero porque los impuestos sobre las rentas de trabajo y el consumo no dan para más hau da

el tema que nos traía hoy aquí que era la denuncia de bildu

prácticas de competencia fiscal entre estados miembros de la unión europea y en este caso en la época del señor juncker cuando estaba de presidente

y es evidente que como el propio representante de bildu nos dice

en su manera intenta hacer competencia fiscal en el doble sentido de la palabra ejercer su competencia fiscal que la tienen y además que sirva para hacer competencia de las empresas que están radicadas en su territorio frente a otras empresas que están radicadas

no nos ha gustado nunca y por eso nosotros planteamos la enmienda exigiendo y pidiendo ya de una vez por todas a la unión europea que lleva más de veinte años tratando de armonizar los impuestos que gravan los beneficios de las empresas para que nos entendamos todos aquí el impuesto sobre sociedades

hemos llegado a un acuerdo en esta materia con todos los demás grupos

mucho más partidarios de que la armonización en europa porque nosotros sí creemos en europa nosotros sí creemos en el euro nosotros sabemos que para que eso funcione se tiene que estar todo el sistema económico armonizado y que no puede haber países yendo por un lado y países yendo por el otro y por lo tanto sí entendemos

tiene que haber una armonización muy superior a la que en estos momentos se está estudiando solo respecto a las bases imponibles nosotros también somos partidarios de que los tipos tengan de una u otra forma cierta armonización en europa todos sabemos aquí se está hablando del tema de luxemburgo

sociedades incluso españolas trasladan su domicilio a irlanda

pagan menos impuestos y eso son más beneficios para repartir a la empresa

y ya que el representante de bildu nos lo mezcla todo la elusión que es el cumplimiento de las leyes intentando pagar menos con la evasión que es el fraude fiscal y con la lista falciani y con todo esto nosotros no podemos

que en estos momentos la diputación de gipuzkoa es una de esas que hace competencia desleal con el resto de administraciones

y hace una competencia desleal y cuando en este parlamento se criticó mucho la reforma del señor montoro y se le llamó amnistía fiscal a la reforma precisamente para evitar la evasión fiscal y sancionar a los defraudadores y nosotros decíamos que hombre algunos se quejan

algunos para regularizarse en el margen que se les daba tenían que pagar el diez por ciento y aquí se pagaba el uno por ciento dos años y medio después resulta

pero si fuera defraudador en españa si fuera residente en territorio común

tendría que pagar el cincuenta por ciento de todo el dinero que tuviera fuera y si fuera residente en gipuzkoa pagaría el uno por ciento

se le llama competencia desleal en cuanto al fraude hoy con la legislación que tiene la diputación foral de gipuzkoa un señor que esté en la lista falciani le sale gratis entonces

de ética fiscal de moralidad de cómo se defrauda y cómo nos roban a todos y los ricos son más ricos y los pobres son más pobres y resulta que cuando alguien tiene

para que eso no sea así no lo hace sino todo lo contrario hombre lo menos que tendría que tener es cierto pudor de venir aquí a hablarnos a los demás

hoy en españa y en algún otro territorio además de gipuzkoa

los mayores beneficiarios que tengan cuentas opacas

donde mejor les sale es siendo residente guipuzcoano pero claro la diferencia es tan abismal entre lo que tendría que pagar un señor que está en la lista falciani

o de territorio común o alavés por poner un ejemplo

que si en sitio por tres millónes de euros en gipuzkoa con cuarenta mil lo arregla

en el resto tendría que pagar más de millón y medio de euros es decir más de la mitad del dinero que tiene y algo tendría que explicar ustedes si este tema de verdad les preocupa tanto este tema de la elusión y la evasión

que ya que tiene competencias en una diputación foral con competencias fiscales

además de venir aquí a hablar usted decía las palabras bonitas podemos

no sé si coincidimos desde luego en los hecho no en los hechos es donde no coincidimos

no coinciden y por lo tanto qué quiere que le diga no nos va a venir a dar lecciones en esta materia por lo menos a nosotros no

porque resulta que donde nosotros gobernamos si se le pilla a alguien defraudando más de la mitad del dinero lo tendría que pagar y en su caso decía el señor juncker con la operación que tenia pagaban el uno por ciento igual que en gipuzkoa hay un defraudador de la lista falciani

lo mismo que usted dice de otros que hacen eso que le parece muy mal

y corríjanlo hombre todavía tienen unos meses antes de que se acaba la legislatura

si lo plantean en la diputación de gipuzkoa pero plantéenlo

hemos llegado a un acuerdo con el resto de grupos del parlamento con el grupo nacionalista con el grupo socialista y con upyd en el que evidentemente rechazamos las prácticas que se han producido en esta materia y le instamos a la unión europea

armónica en todos los estados que si bien respete las competencias fiscales de cada estado prohíba de alguna forma o impida de alguna forma que se haga una competencia desleal o un dumping fiscal

y en este caso nosotros además le instaríamos a la diputación de gipuzkoa a que el dumping en el fraude fiscal que práctica también lo corrija muchas gracias

a los socialistas nos parece muy oportuno que el parlamento vasco hoy pueda pronunciarse sobre la política fiscal europea y sobre el fraude fiscal en europa primero porque es una política sobre la que tenemos competencia nos compete porque

y además también por conciencia porque también queremos que europa tenga una configuración política social ética que pueda ser de convivencia para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de la unión europea

efectivamente estamos ante un escándalo mayúsculo estamos ante un fraude fiscal extraordinario y estamos ante unas prácticas políticas que ponen en jaque a la propia unión europea que ponen en jaque a la decencia de la unión europea y que ponen en jaque también a la máxima autoridad política de esa unión europea juncker es el presidente de la unión europea es a su vez o fue

del país que acogió prácticas fiscales para defraudar para escamotear para reducir

para los ciudadanos y ciudadanas de toda europa porque trescientos ochenta y cuatro multinacionales están afectadas veinticuatro países acogen a esas multinacionales y por tanto este es un fraude fiscal esta es una política fiscal que

al conjunto de la unión europea que juncker en estos momentos con estos antecedentes

no deja de ser una desgracia para la política una indecencia para la política y un problema que tendremos que superar no en vano los socialistas españoles

que necesitaba la unión europea la que podía dignificar la política o la que podía producir la recuperación u otra política distinta

hubo quienes entendieron que sí y ahí está ahí está un presidente de la unión europea que está más que bajo sospecha

y que va a ser imposible que sea un elemento activo para sacar de la crisis a la unión europea

intentando con algunos cientos de miles de millónes de euros tratar de hablar de la recuperación y del estímulo a la economía la realidad es que durante estos últimos diez años no han sido cientos de miles de millónes de euros sino que han sido billones los que se han escamoteado a las arcas públicas la derecha en europa y en los países europeos los conservadores en europa y en los países europeos durante todos estos años de larga crisis provocada

especulativo contra el capitalismo productivo nos han indicado con mucho énfasis que los países no podían gastar más dinero del que tenían que hay que equilibrar las cuentas y han impuesto

esas políticas de recortes de copagos y de repagos porque

porque se estaba trabajando desde lo público por encima de las posibilidades porque alguien gastaba más de lo que ingresaba y cuando surgen situaciones como esta cuando se ve que hay billones de euros que han sido derivados de lo público a lo privado con esas políticas fiscales tramposas

es que si las arcas públicas de los países hubieran tenido los recursos públicos con los que se ha defraudado estaríamos en otra situación tendríamos otros recursos podríamos hacer otras políticas habría otro empleo habría otra atención social habría otras políticas públicas habría otros servicios públicos y otras políticas de igualdad lo que se hace es quitar el dinero a los ingresos pues al final ocurre que no llega que hay endeudamiento recortes siempre en un círculo vicioso que está organizado por los mismos yo creo que hoy hay un elemento significativo en este debate y también en la

que hemos acordado cuatro grupos políticos porque en esa enmienda

cosas de las que estoy hablando se plantean cosas para luchar contra el fraude fiscal se plantean cosas para luchar contra la elusión fiscal para aclarar las cosas para que se investigue para apoyar la investigación para que se pidan y exijan responsabilidades políticas a quien ha estado pero se dice algo que es muy importante para la política vasca y para los debates que hemos tenido también en el último año y medio en esta cámara en esta enmienda se plantea que es necesaria una política fiscal europea que es necesario

un impuesto sobre sociedades europeo que es necesario que tengamos unas mismas

en el conjunto de la unión europea porque si no la desigualdad está asegurada

a estas prácticas de fraude y de elusión fiscal estarían

con debates que hemos tenido aquí hemos estado discutiendo si la fiscalidad tenía que ser territorial si el parlamento vasco podía intervenir en la fiscalidad o debía de intervenir en la fiscalidad hoy damos un salto más aquí hemos hecho debates sobre política fiscal que han unificado parte

en el conjunto del país vasco que luego se ha trasladado a las diputaciones forales que son quienes tienen la competencia desde la perspectiva legal pero con una política fiscal que se ha definido que ha sido unitaria que ha sido mayoritaria que ha tenido muchos apoyos para que se pudiera llevar adelante bueno hoy estamos dando un salto hoy estamos planteando

esa política que hay aquí esa política sobre alguno de los impuestos necesita tener una dimensión europea porque si no estamos en unas condiciones de dificultad y en unas condiciones de problemas para los recursos públicos y también para una competencia razonable y real con

que conformamos la unión europea ha habido episodios de la política fiscal vasca en la que la unión europea ha intervenido ha habido episodios en los que la unión europea ha dicho o no se ajusta

o no se cumplen con los procedimientos europeos las vacaciones fiscales podrían ser uno de los elementos de intervención de la unión europea en la política vasca por lo tanto

interviene sobre la fiscalidad vasca porque la fiscalidad vasca no ha hecho los procedimientos

es razonable que el parlamento vasco también le exija a la unión europea que intervenga en aquello que nos afecta también a nosotros por prácticas fraudulentas

o de subvenciones encubiertas o de como se le quiera llamar para que

los más poderosos sigan pagando menos nosotros nos congratulamos de que sobre esto haya yo diría que prácticamente una unanimidad con independencia de la posición que vaya a adoptar cada uno formalmente aquí en relación a si se apoya

que apoyamos una enmienda que yo creo que recoge lo sustancial lo fundamental lo que es unitario y lo que además es común para todos los grupos políticos para los cinco grupos

que va un poco por su cuenta que quiere diferenciarse que quiere significarse bueno ni tan siquiera eso me parece importante porque creo que

cosas muy parecidas que tenemos objetivos comunes que también sumamos en la perspectiva de que haya una política fiscal europea en la perspectiva de que haya

no se permita estos fraudes fiscales se investigue y se exijan responsabilidades

sea más decente y menos indecente de lo que estamos descubriendo con cosas como estas yo creo que este es el sentir de esta cámara yo creo que es el sentir unánime de esta cámara y a mí me parece importantísimo porque la lucha contra el fraude fiscal

vital de conciencia tiene un componente vital de ética tiene que estar por encima de muchas consideraciones políticas porque en realidad

porque de la política fiscal es de donde se organiza la sociedad desde donde se da servicios y desde donde se da oportunidades a la ciudadanía y todo lo que sea quitar recursos a lo público es quitar oportunidades y quitar servicios

cada vez más hay una alta sensibilidad y será esa alta sensibilidad cerrando posibilidades y oportunidades a paraísos fiscales que pedimos que desaparezcan y a políticas fiscales como estas que también pedimos que desaparezcan y que sus autores asuman sus responsabilidades por eso los socialistas como hemos suscrito la

la apoyaremos pero además estamos muy satisfechos y nos parece que es un avance un paso adelante que este parlamento por encima del papel que representa de la comunidad que representa del espacio que representa

hoy que hace falta una política más abierta más amplia ni más ni menos que de nivel europeo muchas gracias

muchas gracias señora presidenta buenos días a todas y a todos señores consejeros señor

el fraude fiscal está perfectamente definido el fraude fiscal es una forma de evasión de impuestos deliberada que en general es sancionable penalmente el término incluye situaciones en la que se presentan deliberadamente declaraciones falsas

falsos documentos la evasión fiscal también está perfectamente definida la evasión fiscal incluye planes ilegales para ocultar

legalmente obligado a pagar ocultando renta o información a las autoridades tributarias

fiscal la planificación fiscal consiste en la evaluación de alternativas y en la elección de las formas jurídicas más convenientes para reducir

buscando hacer más rentable un determinado negocio y también está perfectamente definida la planificación fiscal agresiva que consiste en aprovechar los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las discordancias entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda fiscal

diversas formas entre sus consecuencias cabe señalar

y la doble no imposición el objetivo según upyd sería tratar de impulsar todas las medidas políticas económicas y fiscales

smith cuando decía que los súbditos oy ciudadanos

en una proporción lo más cercana posible a sus respectivas capacidades de esa máxima depende la equidad o falta de equidad de los impuestos

estamos de acuerdo con esta afirmación y con este objetivo y obviamente tener una fiscalidad justa progresiva

y que sirva para sostener el estado del bienestar y las necesidades del conjunto de la ciudadanía de qué hablamos cuando hablamos del escándalo

que es la base en la que se fundamenta la iniciativa presentada por eh bildu de qué hablamos cuando hablamos de este

hablamos del hecho de que casi trescientos cincuenta multinacionales firmaron acuerdos fiscales secretos para rebajar sus impuestos con el gobierno de luxemburgo al frente del cual estaba juncker en el momento de los acuerdos

en luxemburgo en el caso que nos ocupa están involucradas empresas como pepsi apple amazon ikea y algunas otras

y en las deficiencias de la reglamentación internacional para transferir sus beneficios

o al menos minimizarlo lo máximo posible todas estas empresas fueron ayudadas por la

que obtuvo alrededor de quinientos cincuenta decisiones fiscales vigentes en luxemburgo entre dos mil dos y dos mil diez para beneficiarse de estructuras fiscales complejas diseñadas para crear reducciones drásticas en los impuestos

algunas compañías consiguieron incluso impuestos de sociedades de tan solo el uno por ciento sobre los beneficios que llevaron a luxemburgo y evidentemente

una respuesta europea y una respuesta contundente y también inteligente lo cierto es que en su momento el gran ducado dijo que se respetaban perfectamente las reglas sin embargo alemania enseguida dijo que esto no podía ser así y señaló la injusticia de las decisiones tomadas

para pagar menos y decía que no puede ser que unos pocos se enriquezcan a costa de muchos esto vale tanto para estados como para empresas y efectivamente

de acuerdo con esa afirmación y nos posicionamos en relación con este escándalo también en el parlamento europeo maite pagazaurtundúa exigía a la comisión europea que garantizara la independencia e imparcialidad de las investigaciones sobre el escándalo de elusión fiscal de luxemburgo de nominado

que este escándalo supone un ataque clarísimo contra la unión europea se atenta contra los ciudadanos europeos y contra las haciendas estatales que sufragan los servicios que presta el estado

supone un caso clarísimo de competencia desleal contra todas las empresas que por no tener el trato privilegiado de luxemburgo tienen que pagar tipos fiscales mucho más

afirmaba también que resulta fundamental que los ciudadanos y la sociedad civil puedan conocer toda la verdad sobre este caso y dado que la comisión ha anunciado que investigaría el caso denunciado en las filtraciones decíamos

un actor necesario para que se llevaran a cabo estos pactos de evasión de impuestos decíamos digo que

mecanismos para garantizar la independencia e imparcialidad de estas investigaciones respecto a la comisión de investigación que se propuso y que no salió adelante

la decisión de aprobar o no la petición del grupo de los verdes para crear una comisión de investigación sobre este asunto fue tomada exclusivamente por la conferencia de presidentes órgano que está conformado por los presidentes de los grupos políticos por qué

pues porque se había llegado a un acuerdo con los dos principales grupos políticos para la creación de una comisión especial que no de investigación sobre encargada de analizar los métodos fiscales de algunos estados miembros de la unión europea y que fue aprobada en la misma conferencia de presidentes y llevada al voto en sesión plenaria en todo caso también tengo que decir para aclarar que

becerra nuestras eurodiputadas allí dos de las cuatro que tenemos firmaron la propuesta inicial de los verdes

de investigación y efectivamente upyd apoyaba la creación de esa comisión de investigación no la creación de esa comisión especial sino en concreto la creación de una comisión

luchar contra el fraude fiscal luchar contra la elusión fiscal y luchar contra los paraísos fiscales fundamental defender una política fiscal justa

de la unión europea y desde luego fundamental defender y siempre lo hemos defendido también en este parlamento una política única

única para el conjunto de la unión europea que haga imposible el dumping fiscal y por lo tanto trasladar competencias también en este caso competencias fiscales

parece que no tiene mucho sentido que las competencias fiscales sigan en manos de las juntas generales de los territorios históricos hay que trasladar competencias

hacia arriba para tratar de tener cuanto antes una política fiscal común que impida el dumping fiscal teniendo en cuenta todo esto nosotros hemos presentado

sobre el escándalo de elusión fiscal de luxemburgo denominado

en todo el ámbito de la unión una verdadera unión fiscal y una política fiscal progresiva progresista y justa que incluya medidas ambiciosas de lucha

y la desaparición de los paraísos fiscales y lo mismo proponíamos también para el gobierno de españa y para las tres diputaciones forales también

y a las diputaciones forales a atender y tener en cuenta la batería de medidas planteada por la asociación mayoritaria de los inspectores fiscales que incluían medidas muy interesantes para

el fraude tributario y finalmente proponíamos instar al gobierno a promover la creación de una base imponible común consolidada europea que permita repartir la recaudación del impuesto de sociedades entre países en función de la presencia de la empresa en cada uno de ellos esto último ya fue presentado en su momento

de sociedades del gobierno de españa en todo caso efectivamente hemos llegado a una transaccional que creo que recoge lo fundamental de lo que debería hacerse para luchar

malas prácticas por eso la hemos firmado y por eso la vamos a votar en todo caso sí que habría que señalar para terminar y de algo de esto ha hablado el señor damborenea es que hace apenas dos días leíamos una información muy interesante que

desconocida interesa recordar

son más tolerantes con quienes ocultan bienes en el extranjero

y es algo que es absolutamente cierto su normativa permite a los defraudadores acceder a un lavado barato que ya no tienen los contribuyentes de la agencia tributaria o de la diputación de álava es decir que algo también podemos hacer aquí cerca nuestro

y en lo que se refiere a gipuzkoa por lo tanto hay aquí varios grupos todos excepto upyd que tienen presencia en esas juntas generales y por lo tanto pueden promover la modificación de esas normativas fiscales para impedir esas

un contribuyente que esconda en suiza tres millónes de euros tan solo debe pagar

mientras que con la legislación vigente en álava y el estado el mismo contribuyente tendría que abonar uno coma cuarenta y seis millónes de euros es decir

se deben y se deberían y se deberán tomar medidas en relación a esta cuestión esto también es practicidad política señor representante portavoz
eh bildu está bien hablar de europa hay que hablar de europa pero también se puede hablar de qué es exactamente lo que ustedes hacen allí donde gobiernan eskerrik asko maneiro jauna

agertzea jende aurrean agertzerakoan en la visualización

que con planificación política agresiva como estamos hablando de planificación fiscal agresiva que es la que algunos estados desgraciadamente en europa en la unión europea están haciendo con esa planificación

cualquier cosa antes de salir en la foto con los demás eta horrek casanova jauna

beste alderdi politiko batzuek ere bai pero también los asesores

también todas las personas que llevan corbata estigmatizazio prozesu handi batean eta guk guzti horrekin

tensiones en los contribuyentes perjudicados a título individual que observan

reducen reducen su carga fiscal tratando los beneficios fuera de donde se mientras ellos soportan una carga mayor y tensiones en otras empresas que se ven perjudicadas porque no todas las empresas señor casanova recurren a este tipo de prácticas

no señora gorospe esto no responde a ninguna planificación política agresiva

pero nosotros no planificamos que la fiscalía se querelle contra el tema de hiriko ni planificamos que el flamante consejero le oculte al lehendakari cosas de

por unas malas gestiones anteriores o por unas prácticas no muy recomendables entonces si estáis nerviosos tranquilizaros porque nosotros aquí estamos hablando

y lo que hemos dicho es que no podemos firmar un documento de buenas intenciones de política fiscal con quien en la práctica está haciendo absolutamente lo contrario de lo que está reclamando en este documento y por pura coherencia y no por planificación política agresiva no podemos firmar documentos

contraria a lo que está firmando y contraria a lo que la mayoría social del país demanda

con reproche yo también lo soy pero me parece que está bastante mal informado sobre lo que está pasando en gipuzkoa

porque da la impresión de que gipuzkoa es un paraíso fiscal a medida de los grandes empresarios cuando en realidad el territorio que está siendo vanguardia en la imposición fiscal a los que más tienen con el consiguiente pataleo que a través de estos medios que le he mencionado podrá ser usted consciente pero lamento que haya centrado toda su intervención la práctica totalidad de su intención sobre una premisa falsa

beneficiosa para los evasores fiscales en el caso de que decidan declarar ese dinero pero no es una fiscalidad que bildu haya puesto en marcha si se fija

no han hecho mención a ese supuesto caramelito para echarle en cara a bildu y no lo han hecho por qué porque fueron ellos los que pusieron en marcha

esa norma beneficiosa para los infractores en el marco de la contrarreforma fiscal

y del pnv se volvió a instaurar copiando la fiscalidad de bizkaia y efectivamente dando unas ventajas injustificadas a los evasores

con el voto favorable del partido popular por tanto no es la política de bildu sino la política impuesta por el pp

la responsable de que en gipuzkoa exista ese agujero en la política fiscal que además un agujero contrario a toda la política absolutamente coherente que desde el minuto uno

sobre la premisa de que pague más el que más tiene y además lo está haciendo con buenos resultados

muy bien diseñado recauda un veintisiete por ciento menos de lo previsto y en conjunto

previstos impide que la recaudación de esta comunidad alcance los objetivos previstos en gipuzkoa se recauda lo establecido y en el ámbito del impuesto de la riqueza en las grandes fortunas más de lo establecido a pesar

mentiras mediáticas y que algunos responsables políticos de una forma irresponsable valga la paradoja

eso no es cierto tanto en el impuesto de las grandes fortunas como el conjunto de la recaudación fiscal

sin más deuda y sin recortes se está consiguiendo mantener los servicios sociales y recaudar más dinero y en otros sitios

en el año dos mil once josé luis bilbao nada más tomar posesión de su cargo como diputado general dijo

no se recaudaría más se recaudaría menos porque se perderían domicilios fiscales esa es la política fiscal del pnv no se puede poner impuestos a los ricos porque se van y eso es un error

como se está demostrando en gipuzkoa y por tanto efectivamente no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de política fiscal justa y progresiva

en la diputación y ahí estaba el señor bergara que ahora vuelve a aparecer en una empresa constructora que casualidad trabajaba para la diputación de gipuzkoa cuando el pnv la gestionaba y que además

en un procedimiento judicial y ahí estaba como diputada de hacienda una persona que ahora forma parte de la dirección de confebask

eso es relaciones espurias entre la patronal los partidos y las instituciones eso es lo que estamos denunciando y eso es lo que le lleva a ustedes a hacer una política favorable

pero no en el sentido de generar más riqueza y más empleo sino de incrementar pura y exclusivamente su patrimonio individual porque además y con esto termino

y herederos y por cierto me alegro de que apuesten por la creación de comisiones de investigación ya que el portavoz de su gobierno decía que a veces solo sirven para enredar las cosas pero bueno
en este caso quizás no lo enreden quizás solo enreden las cosas cuando investigan los chanchullos del pnv eskerrik asko casanova jauna

muchas gracias señora presidenta yo voy a discrepar con el señor prieto en una cosa puntual usted dice

y yo le voy a poner de ejemplo algo que hizo el gobierno vasco cuando se creó la inspección pesquera que puso a los mayores depredadores de inspectores de pesca porque eran los que más sabían quizás en este caso el señor juncker que es el que más experiencia tiene o de los que más experiencia tiene porque

sino los anteriores gobiernos también practicando la competencia desleal fiscal con el resto de estados miembros de la unión pues quizás sea el más indicado para ver cómo se corrige esto de una vez y se llega a un acuerdo el representante de bildu

de acuerdos pnv psoe de hace mucho tiempo y de hace muchos años y a los que nosotros

yo le he recordado que no hace dos años en este parlamento con esto de poner a parir siempre al partido popular y al gobierno de españa

amnistía fiscal despectivamente a la reforma fiscal del señor montoro que corregía todo eso y ustedes los primeros y ahí tienen las cositas que dijeron desde esta tribuna sí desde esta tribuna

ni para los empresarios oiga ni para los pequeños no es una desgracia la fiscalidad que tiene cualquier empresario en gipuzkoa

lo que sí le he dicho y se lo repito es que gipuzkoa sí es un paraíso fiscal para los defraudadores de hacienda que es distinto

es para los defraudadores para esos que tienen el dinero fuera y le he explicado los datos y como en gipuzkoa pagando el uno por ciento de los rendimientos que haya producido en los últimos cinco años los tropecientosmil millónes que se tengan fuera se acabó la historia

por cierto donde gobierna el pp en minoría pero que casualidad que esta normativa está aplicada para corregir eso y ustedes

entonces usted me puede decir que la normativa venía de antes sí ya sé que venía de antes y en españa también estaba de antes también estaba de antes y nosotros propusimos cambiarla y nos pusieron todos a parir y la cambiamos y ahora resulta que los que no la cambiaron

porque han querido porque otras normativas bien que han cambiado bien que han cambiado por ejemplo el patrimonio mal llamado como lo llamen ustedes esas sí que las han cambiado claro claro es que cuando han querido y lo que han querido lo han cambiado

pues bien aquí cada uno que responda de lo que responda pero lo que no se puede venir aquí es a echarnos en cara a los demás

adalides de la lucha contra el fraude y resulta gipuzkoa territorio comanche en europa verdad paraíso fiscal para los defraudadores no para los empresarios ni grandes ni pequeños y en bizkaia igual pero ya sabemos de dónde viene y por qué viene y por eso le repito que en fin que queda muy bien

en algún caso pero es evidente que en los hechos no coincidimos y yo he le he propuesto en mi anterior intervención

que se lo apoyamos pero plantéenlo si es que tienen intención de verdad de luchar contra el fraude fiscal y de que no haya defraudadores que salgan beneficiados porque trasladan su beneficio pues por ejemplo de vitoria a san sebastián

y entonces en vez de pagar más del cincuenta por ciento pagarían el uno por ciento

porque se estaría detrayendo dinero que beneficia a los ciudadanos y para pagar los servicios de los ciudadanos en otros sitios de españa

o en otro territorio vasco como puede ser álava es algo tan simple como eso todos sus discursos se los aplican a la normativa que tienen en gipuzkoa para combatir

pues empiecen a mirarse por sí mismos empiecen a mirar qué están haciendo empiecen a mirar qué legislación tienen y dejen de dar lecciones a los demás copien cópienos

si tenemos el ánimo de sumar y si tenemos el ánimo de mirar hacia delante porque si nos enredamos o si utilizamos

pues probablemente lo que puede ser un impulso de esta cámara se convierte en una mezcla de quizás impulso pero también de más cosas a mí me parece una broma de malísimo gusto decir que junckers

para liderar la unión europea y para enfrentarse al fraude fiscal porque ha hecho tanto ha ayudado tanto que sabe tanto cuando esa ayuda de fraude fiscal que ha hecho el señor junckers una ayuda que se ha convertido en drama en europa en drama de paro

en drama de inmigración en infinitos dramas de desahucios de no atención a personas enfermas

para muchas personas porque no ha sido otra cosa que detraer cerca de diez billones de euros durante todos estos años que esas multinacionales

podría ser también bárcenas el director de prisiones en españa porque como conoce muy bien la cárcel

en asuntos serios y que cuando se utilice la ironía

en segundo lugar señor casanova yo no voy a aceptar este aire de superioridad ética que usted quiere dar

situándose en el lado de la pureza porque fíjese que estamos haciendo un debate sobre la fiscalidad y el fraude fiscal que tiene retrospectiva

que hablamos de varios años en los que se ha estado planteando ese fraude si a usted le preguntáramos por otros tipos de fraudes que los hay y en el país vasco

ni diría algunas cosas porque la extorsión el impuesto revolucionario y muchas más cosas están ligadas ya no al fraude fiscal

con los recursos económicos también tiene que ver con y con las dificultades y las oportunidades que se ha hecho perder a este país además también

humildad mucho que callar sted quizás además más

ponerse en algún plano de superioridad moral o ética en esta cámara enseñe su currículum enseñe su vida y enseñe su hacer veremos cuál es esa superioridad moral y por último señora gorospe usted decía y hablaba de un impuesto para europa único

usted ha dicho armonizado equivalente

gustavo adolfo béquer cuando preguntó aquello de qué es poesía

de la imposición fiscal bildu está en la vanguardia de la imposición punto está en la vanguardia de la imposición no en la vanguardia de la imposición fiscal como usted dice esan duzu casanova jauna urduri ikusten gaituzula

juego limpio ese es uno de los valores que en deporte escolar pretendemos transmitir a todas las niñas y niños

que practican deporte además de porque es un hábito de vida absolutamente saludable

nos invitaría a promocionar promover y practicar pero es muy importante en el juego

en el campo de juego se puede defender el juego

lo importante es participar y no ganar pero uno puede dar

defendiendo su posición defendiendo su posición y con juego limpio trabajando teniendo buena estrategia conociendo al adversario teniendo claro cuál es el objetivo teniendo claro cómo se puede actuar

que es la de lesionar al adversario es la de horadar

de ganar el juego con la primera posibilidad que es la que en deporte escolar se procura transmitir a nuestras niñas y a nuestros niños

eta egin eta egin eta jarraitu joko garbiagaz pero esa estrategia parece que no les funciona o se ven incapaces de poder seguir en este partido poder seguir

defendiéndose con sus propios recursos con sus propias fortalezas con sus propias habilidades y optan por la segunda estrategia lesionar al adversario y eso tiene muy poquito de ético por lo que nosotros estamos enseñando en las escuelas y en otros ámbitos un dato objetivo comparando el impuesto de patrimonio anterior y el impuesto

riquezas que ahora bildu ha puesto las grandes fortunas verdaderamente

que además han obtenido esa riqueza esa fortuna por herencia no por trabajar no por producir

con la rebaja del tipo marginal se ven beneficiadas y pagan mucho menos y eso objetivo un ejercicio fiscal matemático un cálculo sin más beste barik ez dakit berriro

buenos días señorías gracias presidenta bien

otro error muchísimo mayor y esto es exactamente lo que ha hecho el gobierno del partido popular en ese imparable afán privatizador de los servicios públicos

un primer momento parecía un empecinamiento personal den anterior ministro de justicia que consiguió concitar la oposición

se ha consolidado como la evidencia y la confirmación de un despropósito el debate que vamos a sustanciar hoy no es nuevo de hecho ya lo tuvimos el año pasado concretamente exactamente hará mañana un año en que este parlamento con los votos de todos los grupos parlamentarios

upyd aprobó una enmienda transaccional en la que se reclamaba

del anteproyecto que ponía la llevanza del registro civil en manos de los registradores

y se posicionaba a favor del registro como lo que ha sido hasta ahora un registro público gratuito y

de nosotros que día sí y día también se casa se divorcia adopta tiene hijos necesita una fe de vida se muere o quiere heredar y para ello acude a su registro

y un funcionario le facilita cualesquiera de esos documentos o certificaciones que desee sin cobrarle nada de nada y va a dejar de ser así

a otro de tantos desmanes a los que nos viene acostumbrando

a partir del quince de julio señorías de eso nada de nada serán los registradores de la propiedad y mercantiles quienes se encarguen de la llevanza del registro

en manos privadas lo que hasta ahora estaba en manos de funcionarios públicos porque los registradores no señorías no son funcionarios públicos y aunque se repita lo contrario a macha martillo y como un mantra

ni en verdad ni en lo que la sociedad necesita ni se va a creer porque la privatización de una institución pública como la del registro civil que supone también

a su supresión no se sostiene con ninguna de los argumentos que contiene

que la consagra en su larga farragosa y autocomplaciente exposición de motivos así que como tienen absolutamente claro todos y cada uno de los operadores jurídicos

para defender lo indefendible eran los que consolidaban la motivación de la ley de dos mil once que se pretende enterrar traducido al esperanto la ley socialista que se consensuo con todos los grupos del arco parlamentario ya consagraba la desjudicialización

estaba realizada y el funcionamiento electrónico en marcha también estaba instituida la demarcación registral con una atribución territorial

atendiendo a las necesidades poblacionales y a la estructura competencial propia de las comunidades autónomas así que de racionalización y modernización de nada señorías eso ya era un hecho con la ley del registro del dos mil once ustedes los señores del partido popular utilizan el concepto de racionalización como si fuera la panacea del buen hacer de lo que toca hacer pero el contenido de racionalización no tiene un contenido el concepto de racionalización no tiene un contenido propio por sí mismo sino solo en relación

y la adecuación de los medios para conseguir esos fines y en esto la ley del dos mil once era muy expresiva muy muy expresiva al conformar en un registro civil al servicio del ciudadano que lo que hacía

cargas administrativas y consagraba el principio de gratuidad quién asegura señorías que la entrega de los registradores supone un avance en racionalidad quién asegura señorías la gratuidad de ese servicio nadie absolutamente

nadie nadie nunca se ha avanzado señorías poniendo en manos privadas servicios públicos

alejando los servicios públicos de los ciudadanos y esto es lo que va a pasar sí o sí con la privatización del registro y la supresión

y qué pasa señorías con las inversiones realizadas hasta ahora no se explica en ningún momento en ningún momento cómo

compensarse al estado la inversión pública ya realizada

dónde se va el valor añadido dónde se va el coste público en definitiva en este asunto ganan los registradores y pierden los ciudadanos en cuanto al mantenimiento del registro dentro de la administración de justicia

de nuestros funcionarios encargados del registro qué pasa con esos puestos de trabajo qué pasa con esos empleados públicos perfectamente formados capacitados

que son sí esto sí funcionarios públicos sujetos a exigencias de confidencialidad y seguridad en la protección

quién garantiza su continuidad quién garantiza una prestación de servicio sujeto

el empleo público y por eso en el punto tres de esa enmienda de transacción que hemos firmado con bildu establecemos lo siguiente el parlamento

a que en el supuesto de la definitiva implantación del modelo previsto en la ley ciento veintiocho barra dos mil catorce de quince de octubre mantenga el compromiso de sostenimiento del empleo público

al registro civil y planteando en su caso un plan de readscripción con el fin de reubicar los efectivos existentes

pero esto tendría que ser señorías una última opción porque lo que estamos pidiendo también es que el gobierno se moje que el gobierno se moje y negocie que negocie

y ejecución o un título habilitante necesario que permita garantizar la permanencia de la institución del registro en sede de administración de justicia no vale con que el gobierno diga que quiere competencias con el gobierno diga que exige competencias no vale con que siempre se diga es que no me las dan

no hay que trabajar y eso es lo que le estamos pidiendo al gobierno

con el punto cuarto de nuestra enmienda transaccional en definitiva señorías voy a ir acabando porque yo creo que de este asunto ya hemos hablado largo y tendido y además creo que las posiciones de todos los grupos están claras sobre todo en lo que tiene que ver con la defensa

en definitiva de eso de defender lo público se trata de defender la justicia de proximidad se trata de defender el derecho de la ciudadanía a los servicios en condiciones de igualdad y todo eso es lo que recogemos en nuestra parte propositiva

parte el apoyo del resto de los grupos y no me queda más que agradecer a estos grupos
su disposición para muchas gracias eskerrik asko gallastegui andrea

sí gracias presidenta estamos básicamente de acuerdo con la iniciativa original

planteados por la portavoz socialista con lo que inicialmente se proponía al menos en la mayor parte de esta iniciativa y también en la mayor parte de lo que se propone en esa transaccional que ha firmado con eh bildu como luego explicaré efectivamente no estaríamos de acuerdo

original o con el cuarto punto de la transaccional finalmente firmada necesitamos argumentos de peso para votar a favor

transaccional es decir no basta con decir que esta es una competencia que nos corresponde porque sí sino que creo que hay que argumentar y dar datos convincentes y contundentes para explicar que en el caso de que esa competencia pudiera ejercerse desde euskadi

mejor iba a beneficiar al conjunto de la ciudadanía esto es lo que yo quiero decir en relación al punto cuatro por lo demás ya digo en la filosofía estamos de acuerdo con lo que se propone y así también lo hemos argumentado nosotros de los diputados efectivamente el servicio prestado por el registro civil es un servicio esencial para la ciudadanía y cambiar esta gestión de manos y en concreto derivarlo

puede traer consecuencias tanto directas como indirectas muy graves para la ciudadanía

de la famosa ley omnibus llegando incluso a presentar junto con el grupo socialista y el grupo de la izquierda plural

contra aquel decreto ley este decreto ley introdujo ciertas modificaciones que afectan al registro civil en primer lugar establece una prórroga de la entrada en vigor de la ley veinte barra dos mil once de veintiuno de julio del registro civil hasta el quince de julio

otra de las modificaciones más relevantes es la modificación propuesta en la disposición adicional vigesimoprimera que mantiene que el servicio de registro civil seguirá siendo gratuito pero no se presenta en ninguna memoria económica que acredite cómo se podrá mantener gratuidad y por otro lado la disposición vigesimotercera habla de los aranceles parece ser que el servicio se pagará a cargo de los aranceles derivados de la prestación del servicio por parte del registro mercantil es decir que en vez de forma progresiva que es como se costea ese servicio actualmente

es un nuevo lastre al crecimiento de las empresas ya que finalmente parece que serán ellas las que tengan que costear el servicio prestado por el registro civil y los costes que de él puedan derivarse el veintidós de julio de dos mil once se publicó en el boletín oficial del estado la citada ley veinte barra dos mil once de veintiuno de julio del registro civil

de tres años en ese texto legal se prevé la implantación de una oficina central del registro civil y una oficina general del registro civil en cada comunidad autónoma y otra más por cada habitantes es decir se plantea una organización que nosotros consideramos alejada de los ciudadanos

lo que podría ser razonable si se mantuviese la eficiencia del servicio

a la ciudadanía sino que además con la entrada en vigor del real decreto ley ocho barra dos mil catorce se plantea la entrega del registro civil a los registradores

a tareas propias de los registros civiles serán dedicados a otras tareas en las que la justicia sufre notables retrasos y falta de recursos en nuestra opinión esta propuesta tampoco tiene ningún sentido las personas encargadas del registro civil deben ser los profesionales del mismo

para la realización de esa labor y renunciar a esto supondría la pérdida de un capital humano cualificado y con una gran experiencia que ha venido desempeñando correctamente esa

protegido por el título primero de la constitución española

al entregar a particulares sujetos que no tienen la condición de funcionarios del estado la llevanza del registro civil que incluye la gestión de datos de carácter personal por otro lado la presencia de oficinas del registro mercantil solo estaría garantizadas en las capitales de provincia por lo que generaría

que vive alejada de las capitales aunque se habla del mantenimiento de la gratuidad de la no variación

arancel a los registradores que gestionan un negocio enteramente privado beneficiándose de un monopolio con base legal cedido por el estado siendo una excepción en toda europa

con un sueldo público como hasta ahora había venido realizándose en españa

a cargo de funcionarios de justicia la desaparición del servicio público del registro civil es el primer paso para la desaparición de los mismos

son en nuestra opinión un elemento indispensable para garantizar la justicia de proximidad la consecuencia principal de la privatización del registro civil

en beneficio de unos pocos sin una necesidad real aparente se modifica la prestación de un servicio pudiendo ocasionar por lo tanto consecuencias negativas a la ciudadanía por tanto y en conclusión nos mostramos favorables a la iniciativa aunque consideramos innecesario el punto tres de la iniciativa o el punto cuatro de la finalmente enmienda transada pensamos que habría que estudiarlo y desde luego en el marco de la constitución española y presentar argumentos de peso que sustenten esta propuesta es decir

con datos y argumentos que el traslado de esta competencia iba a suponer beneficios al conjunto de la ciudadanía nosotros no lo vemos y por lo tanto

punto cuatro tenemos ejemplos más o menos recientes ue por cierto luego lo debatiremos con el tema de los inspectores donde tras la realización de la

el resultado ha sido muy perjudicial para el conjunto de la ciudadanía por lo tanto transferencia de competencias porque sí no no lo compartimos y no lo vemos ya digo que por lo demás estamos de acuerdo con la filosofía de esta iniciativa

se propone lo cierto es que ayer mismo en el pleno de control en el congreso de los diputados el grupo socialista le hizo una pregunta en relación a esta cuestión

negó tajantemente y absolutamente que el gobierno tuviera ningún tipo de intención de privatizar el registro civil

qué es exactamente lo que se pretende o si lo que se pretende en última instancia es engañar al conjunto de la ciudadanía porque lo cierto es que apenas unas horas después distintos sindicatos os sindicatos en justicia

sobre la privatización del registro civil y acusaron

en relación a que se hubiera llegado a algún tipo de acuerdo con las organizaciones sindicales sobre la plantilla

posicionamos claramente en contra de la privatización de los servicios públicos y en concreto de la privatización de este servicio público que hoy debatimos por lo tanto nosotros estamos de acuerdo en general

ocho barra dos mil catorce errege dekretu legeak eta

adecuación a la llevanza del registro civil por los registradores de la propiedad y mercantiles ezin da argiago esan aurtengo

popular creo que ha quedado en evidencia cómo han operado

y antes de que siquiera entre en vigor contradicen sus estipulaciones

la operación en disposiciones adicionales de otras leyes que versan sobre medidas de crecimiento competitividad y eficacia es decir por la puerta de atrás

no podían aducir problemas en la aplicación de aquella ley que pasará a la posteridad en perpetua vacacio legis dejando en evidencia

de quienes ustedes señoras y señores del pp quieren cubrir mediante esta reforma

en prebenda que solo favorezca a unos pocos someter a arancel unos trámites que son obligatorios para más gloria de una minoría

esas son las bases para privatizar el registro civil honen kontra agertzeko hondamendi hau konpontzeko

quieren ir a otros destinos porque tienen miedo de que el que ahora están ocupando sean suprimidos ulergarria da hau da egoera

eta lau gauza eskatuko ditugu suspensión de los efectos de esta ley reclamación

aquí mantenimiento de la plantilla actual tercero traspaso y asunción de las competencias no me preocupa tanto en qué términos lo estamos planteando y señor maneiro no es que tengamos un

porque el problema no está en si se gestionaría mejor o peor el problema es si se puede o no se puede en ese estamos porque yo

se gestionará mejor si lo podemos gestionar nosotros tal y como hoy en día y no ante las perspectivas

o no podemos hacerlo y me da la sensación que ante esto cruzarse de brazos es la peor de las opciones

bai bilkura honetan bai iazko otsailaren hogeian izandakoan para nuestro grupo el primer aspecto muy importante en el que hemos de incidir

debe seguir siendo pública y gratuita incluso el real decreto ley

determina que el servicio será gratuito ahora bien sin determinar cómo ni a costa de quién por lo tanto se vuelven a generar nuevas incertidumbres dicho esto

desjudialización del registro civil entendida como que salía del ámbito jurisdiccional pero no del ámbito judicial y a la vez no designaba quién se iba a encargar de su llevanza y tras la vacatio legis de tres años establecida el real decreto ley

establece que serán los registradores de la propiedad y mercantiles los encargados de su llevanza

y muchos rumores como decía la señora llanos en el pleno del año pasado aquí se ha confirmado aquello de que cuando el río suena en este caso sonaba mejor dicho

inconvenientes algunos han mencionado pero para nosotros los principales son en primer lugar las molestias

ya que partimos de una situación en que tenemos el registro civil en los juzgados de primera instancia y en doscientos treinta y ocho

y vamos a pasar a una situación en que no hay doscientos treinta y ocho registradores mercantiles por poner el ejemplo que ponía la señora otadui en el pleno anterior en bizkaia hay veintiuno registradores de la propiedad y

en bilbao por lo tanto obligamos a la ciudadanía a desplazarse para la realización de estos trámites básicos en segundo lugar también

no lo sabemos todavía dentro de esas incertidumbres pero es evidente que si esto se pone en vigor van a quedar vacíos de funciones

a los ciudadanos de la administración de justicia y también nos preocupa esa indisponibilidad del departamento de justicia del gobierno vasco sobre los medios personales y materiales

también nos preocupa la garantía de la privacidad de los datos registrales ya que los empleados de los registros de la propiedad y mercantiles no son funcionarios públicos cuál es nuestro planteamiento a este respecto pues tal y como hemos venido manteniendo nuestro planteamiento

es que el registro civil se mantenga en el ámbito judicial pero desjudicializado y que su llevanza sea encomendada a los secretarios judiciales cuya transferencia

en su defecto si esa transferencia no se quiere realizar que

no son cuerpos judiciales no ejercen la función jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado

en el ámbito de la administración de justicia entendemos que solo de esta manera seguiremos teniendo competencias en esta materia

la prestación de un servicio público y gratuito consiste en residenciar la llevanza del registro civil dentro del ámbito judicial que la comunidad autónoma del país vasco ostenta la competencia en materia de provisión de medios personales y materiales a la administración de justicia en los términos establecidos en la sentencia

por eso en nuestra enmienda a la totalidad establecíamos

haciendo hasta ahora que el registro civil se mantenga en el ámbito judicial en cuanto al tema competencial que se ha planteado en la proposición no de ley aprobada el veinte de febrero del años pasado a instancia del grupo socialista

en materia de registro civil de conformidad con lo previsto en la ley veinte barra dos mil once tras la comparecencia del señor consejero erkoreka el pasado veintinueve de octubre quedó meridianamente claro

esta materia incluso nuestra portavoz reconoció que no fue muy acertada

en algún otro caso se ha hablado de nosotros sabemos reconocer nuestros

creemos que quedó bastante bien claro pero hoy se vuelve a incidir sobre lo mismo en la transaccional firmada por el partido socialista y eh bildu hasta la ley veinte barra dos mil once ningún problema había en esta materia como ya se ha comentado se estableció una vacatio leguis de tres años hubo un cambio de gobierno en madrid y un cambio de planteamiento y previamente con una gran incertidumbre al respecto

en sus estatutos de autonomía de acuerdo con sus estatutos de autonomía y las leyes

tres grupos de comunidades autónomas las que tienen atribuidas competencias en materia de justicia y ejecutivas de registro civil que son cuatro cataluña aragón andalucía y extremadura aunque esta última no tiene todavía las transferencias de medios

y las que no tienen atribuidas competencias en ninguna de estas dos materias la ley veinte barra dos mil once se alegaba en aquella pnl que pudiera servir de título habilitante para asumir esta nueva competencia hoy también se hace referencia

para conseguir esta transferencia de la materia ejecutiva de registro civil a este sentido son claros los informes jurídicos que

en el año dos mil once sobre esta materia por tanto queda claro que es imposible enganchar directamente la competencia a través de esta ley ordinaria del estado

con lo que ello conlleva y para este tema en concreto actualmente y en este sentido y ante su insistencia en la solución de la competencia de ahí nuestro punto último en la enmienda de totalidad en la que

en esta cámara se está desarrollando una ponencia de autogobierno que aunque es para otras cosas pues si realmente esta materia se cree que es importante se podría plantear a este respecto iniciativas nosotros tenemos claro cual sería

vasco que salga de esa ponencia de autogobierno pero cada cual que plantee en esa ponencia lo que entienda respecto a la reforma estatutaria y la segunda alternativa sería una ley orgánica de transferencia o delegación del artículo ciento cincuenta punto dos de la constitución española la competencia sigue siendo del estado y es una delegación una concesión graciosa del estado

del gobierno español con la mayoría absoluta al gobierno popular pues yo creo que también es una materia complicada por no decir imposible y a pesar de todo no obstante y en estos ambos casos de forma estatutaria a pesar de que hiciesemos

concediese esa transferencia con el modelo finalmente propuesto por el gobierno español va a dar igual

no van a tener ninguna función en materia registral salvo almacenar los libros de registro una vez que se proceda a su registro informático a su sistema registral electrónico

el gobierno es cierto que quiere competencias que sirvan en aras a lograr un mayor autogobierno eso es evidente pero quiere asumir competencias que sirvan para algo que sirvan para mejorar las condiciones de vida y

el real decreto ley ocho barra dos mil catorce refrendado por urgencia por el congreso de los diputados el cuatro de agosto del dos mil catorce y posteriormente tramitado como proyecto de ley el quince de octubre

con todo ello con todo este planteamiento ya hemos dicho para las comunidades autónomas con competencias ejecutivas o no y para las que

como decía el consejero en su comparecencia a meros almaceneros de los libros registrales

del veintinueve de octubre había quedado claro en la que bildu demandaba omo hoy hace aquí también una estrategia para superar las circunstancias adversas decía y quedó muy claro cuál es la estrategia del gobierno vasco que es muy clara y es la que entendemos que hay seguir la única forma en que se pueden retener las atribuciones

es desjudicializándolo pero manteniéndolo dentro del ámbito judicial sin depender de los jueces con ello nos permitiría seguir ejerciendo las competencias que hasta ahora se han ejercido limitadas ambién es cierto dentro de la administración de justicia respecto al registro civil como no voy a tener tiempo ahora en el segundo turno me reservo para los pasos ecía el señor

eh bildu instaba a dar pasos y bueno pues le diremos cuáles son los pasos que se han dado que los conoce y cuáles son las alternativas que se plantearon en esa comisión

y finalmente si esto se llevase a cabo si este modelo acaba implantándose lo que pedimos al gobierno vasco es que mantenga su compromiso de sostenimiento del empleo público adscrito al registro civil tal y como ha venido manifestado de forma reiterada hasta ahora

el diecisiete de julio posterior declaración institucional comparecencia el veintinueve de octubre planteando en su caso y en su momento un plan de readscripción con el fin de reubicar los efectivos existentes en otras unidades y servicio de administración de justicia

gallastegui de que la transacción a la que han llegado eh bildu y el partido socialista que espera que tenga el apoyo del resto de grupos la parte que nos corresponde también mencionar que algo también hemos tenido de negociación

hemos transado pero hay uno en el cual no hemos llegado a acuerdo que es el punto de la asunción de las competencias que no nos van a servir para nada

pero en el punto primero hemos incluido no solo el real decreto ley ocho barra dos mil catorce sino también la ley que realmente es la que convalida el decreto ley y hemos incluido instar al gobierno al compromiso por la sostenibilidad del empleo público besterik ez

efectivamente señora gallastegui volvemos a debatir en esta cámara el asunto del registro civil volvemos a debatir sobre una cuestión

en una muestra más por parte de algunos grupos de convertir en este parlamento en la segunda instancia de la cámara baja lo que no consiguen allí

para debatir no sé igual es que esas victorias morales reconfortan pero donde realmente se decide este tema es en el congreso en la exposición de su proposición

no podemos estar de acuerdo en absoluto como esa afirmación grandilocuente de que el partido popular deja en manos privadas el registro civil se vuelve a mezclar y otros grupos también lo han hecho el tema de los juzgados

judiciales con este debate se hace referencia a la pérdida de puestos de trabajo a la eliminación del carácter gratuito a la falta de seguridad en la protección de datos

no lo entendemos muy bien si se refiere al tema de que los registradores

en un párrafo de su exposición de su justificación reconoce usted señora gallastegui que los registradores son funcionarios públicos para en el párrafo siguiente negarle dicho carácter

porque que de un párrafo a otro se cambie de opinión es realmente sorprendente algunas cuestiones que se ponen en esa proposición y que se han puesto de manifiesto aquí han sido rebatidas por el propio ministro de justicia

del debate del proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la administración de justicia y registro civil y con ocasión de ese debate como decía el señor catalá desmontó algunas de las afirmaciones que ustedes aquí hacen como verdades taxativas

llevaba unos modos administrativos y unos sistema tecnológicos propios de aquella época y que

y con un amplio consenso se modifica la ley de registro civil una de las acusaciones que se hace es que el gobierno del partido popular lo que pretende es una contrarreforma del esa ley del dos mil once en absoluto lo que pretende el gobierno es de una visión pragmática es de una visión posibilista desde una visión realista precisamente es la implantación de esa ley

del registro civil y que mejore y modernice el servicio que consiga los objetivos precisamente que esa ley tenía porque el propio ministro puso de manifiesto en el congreso que en la memoria del consejo general del poder judicial el cincuenta por ciento de las quejas y reclamaciones que se reciben

al funcionamiento actual de los tiempos de espera y de los horarios de atención al público y por ello el propio ministro reconoció las bondades de la ley dos mil once al intentar

a gran parte de los problemas mediante una modificación en profundidad y que fuera más acorde con la realidad social política y tecnológica

el gobierno del partido popular continuar diseñaba un registro civil único para toda españa informatizado accesible y que pudiera ser consultado por otras administraciones públicas

y que se dejase el sistema de secciones para pasar a ser un registro de personas identificadas con un código personal es verdad que

hasta el pasado año dos mil catorce el problema es que como en tantas otras leyes hechas por el gobierno socialista se hacía la ley y luego ya el dinero

no debió proveer entonces no llevaba aparejada ni memoria económica ni recursos con lo cual todo eso había que ponerlo en marcha señora gallastegui

de dos mil quince en esa ley a la que yo le hacía referencia

que se presentó en diciembre se establece el carácter público gratuito como

de las prestaciones del registro civil tanto para los ciudadanos como para las administraciones públicas esa misma ley es cierto que dice

pero eso no significa no supone una amenaza para el empleo de los funcionarios públicos es más el propio ministro ha trabajado con los sindicatos para que

mediante una reorganización y reasignación de efectivos a otros órganos de la administración de justicia lo que pretende esa ley

y no se trata de una contrarreforma por mucho que se insista sino de desarrollar la ley en vigor una ley que sacaba del ámbito jurisdiccional el registro civil que suponía una desjuicialización del servicio aunque ahora algunos

y que fueran funcionarios distintos de los que integran el poder judicial los que fueran a llevar al registro es verdad que al principio se pretendió una corporación de derecho público y finalmente esta idea ha sido abandonada

es ser sustituida por una plataforma electrónica puesta a disposición del ministerio de justicia por el colegio de registradores

precisamente para poner esto en marcha y la estructura que fija esa ley

las oficinas consulares y las oficinas de los registros de la propiedad y de los juzgados de paz que no desaparece porque también el propio ministro se ha comprometido a que no van a desaparecer los juzgados de paz yo comprendo que a veces bueno pues las fiabilidades

dirigentes por experiencia propia no le dan crédito a las palabras de un ministro pero créame que se ha comprometido y que en algunos grupos

los ciudadanos un nuevo registro civil y bajo la supervisión del ministerio de justicia que no

en un servicio que no tenga carácter público y no va a tener ningún coste ni para el estado ni para los ciudadanos y por ley como digo está garantizado el carácter gratuito del mismo

en las que se insiste como usted decía señora gallastegui en alusión a lo que usted mismo decía es a fuerza de repetir

pero no no y una de las cosas que se pone de manifiesto una y otra vez es que que lo lleven los registradores

que no tiene nada que ver que el carácter público del servicio no depende de si lo llevan los registradores o no y además por mucho que usted diga que no que ya no sabemos si es que sí o que no en función de cómo le he dicho que

se lo quita pero le diré que según el artículo doscientos setenta y cuatro de la ley hipotecaria son funcionarios público los registradores a todos los efectos legales son funcionarios

funcionarios públicos los encargados de llevar el registro civil bajo la supervisión como digo del ministerio de justicia que va a ejercer en cualquier caso la potestad disciplinaria por tanto a ver si queda claro al señor

yo tengo más suerte será un registro civil gratuito llevado por funcionarios públicos supervisado y controlado por los poderes públicos también es cierto

al diálogo al acuerdo a introducir modificaciones e introducir ajustes y eso llevó a que a algunos grupos no pusieran no interpusieran una enmienda de totalidad precisamente porque en pos

van a presentar enmiendas a la misma se solicita

si es que el gobierno vasco ya se ha opuesto pero ya se ha opuesto al registro civil

si el gobierno vasco se opone por sistema si los martes del señor erkoreka son lamentaciones continúas contra el gobierno de españa lamentaciones continuas con el registro civil y con los temas que no son el registro civil eso es lo que ocurre martes tras martes con lo cual se podía haber ahorrado esa

de suyo la iba a hacer el señor erkoreka si ya lo puso como ha dicho el señor

lo que en comisión el señor erkoreka nos contó miméticamente yo lo que creo esto se tiene que debatir donde se tiene que debatir que es en el congreso de los diputados que allí se tienen que hacer las aportaciones que se tienen que hacer y yo ya no sé si algunas de las manifestaciones que están establecidas en la ley en un precepto legal que es el carácter gratuito y público del servicio pues no sé si es que también van a exigir un aval pues si es que ahora para el cumplimiento de las leyes también van a exigir avales

señor maneiro en dos palabras efectivamente como ha dicho el representante del pnv

pero eso no es una concesión graciosa como dice el representante nacionalista eso es una cuestión de negociación y

porque como usted ya sabe además una vez que dentro del ámbito competencial está una competencia bien sea por ley

de la propia reforma estatutaria esa competencia sobre esa determinada materia

establecen al final hace que eso se constituya como bloque constitucional

a cualquiera de ellas en este caso una ley ordinaria sería inconstitucional si quita las competencias ejecutivas del registro civil de la comunidad en este caso de la comunidad autónoma vasca por ahí yo creo que ha quedado claro al final de lo que se trata es de llegar mayor autogobierno por vías diferentes pero en definitiva la posición que nosotros planteábamos es que es la negociación en este caso con el gobierno de españa no una concesión graciosa sino la negociación lo que va a hacer que euskadi tenga mayor autogobierno siempre bien

efectivamente las victorias morales reconfortan pero la soberbia deja siempre un regusto amargo y es por eso por lo que hay que ir muchas veces de la soberbia que ya hemos hablado usted y yo más de una vez tenemos y efectivamente reconfortan

de previsión y de provisión y cuando hablamos de prevención es porque sabíamos perfectamente que esto iba a pasar exactamente igual que pasó con las tasas que por cierto iban a ser para sufragar la justicia gratuita y ni están ni se les esperan y no solamente ni están ni se les esperan sino que claramente se dice que es que no teníamos ninguna obligación

determinado no existe afectación del ingreso recaudado por la tasa oiga

porque aquí por activa y por pasiva se nos están diciendo cosas que luego el partido popular nunca cumple no sé si voy a ser suficientemente

no solamente el registro civil casi todo vamos a ver funcionarios públicos no son funcionarios públicos usted sabe perfectamente que el artículo doscientos cuarenta y siete de la ley hipotecaria de mil novecientos cuarenta y seis es decir once años antes que la del registro civil

actualmente hay sentencias múltiples de la comunidad europea que usted conoce

registradores no son funcionarios públicos cobran arancel organizan su es decir cobran como un autónomo digamos

para intentar en fin que hubiera una readscripción de los efectivos que van a salir del registro eso no dicen los sindicatos no sé con qué sindicatos

ayer mismo le llamaron mentiroso diciendo que no había llegado a ninguna acuerdo

de las organizaciones sindicales en relación con la plantilla tras la privatización hay cosas que es complicado decir en una tribuna porque el papel las palabras se las lleva el viento pero el papel hay veces que sí lo aguanta todo

y sobre todo de lo que hace después de decir porque hasta hoy el

ha dicho por activa y por pasiva que no va a cobrar nada por los registros también dijo que iba a pagar la justicia gratuita con las tasas judiciales

no es la palabra sino los hechos los que tienen que llevar en realidad a creer no solamente creer

sino apoyar

es manifestar la realidad de que

cuando efectivamente hay por detrás una justificación una motivación si yo fuese una personas bastante menos educada de la que soy podría decir cuáles son los razonamientos o las condiciones o las motivaciones espurias que hay detrás

grupo de autónomos

que cuyas quejas no son el ochenta por ciento ni muchísimo menos y en la mayor parte del resto de españa las quejas no alcanzan ni el nueve por ciento como se ha establecido

sí voy terminando presidenta hay que decir las cosas como son señora llanos porque lo bueno es que el tiempo pasa

las cosas se ven y mientras tanto por el camino sin estas actividades de prevención de previsión y

derechos perder derechos perder servicios públicos

pero seguimos sin recibir argumentos contundentes y claros para votar a favor del punto cuatro

a que promueva e impulse negociaciones para el traspaso y asunción de las competencias de gestión y ejecución en ese sentido nos parece más razonable

asunto se pudiera debatir en la ponencia de autogobierno y no solamente en la ponencia de autogobierno sino incluso en el marco de una posible reforma constitucional nosotros no

aquello que se dice que es que cuanto más autogobierno mejor no estamos de acuerdo con eso depende

otras deben estar en los municipios otras debe tenerlas el gobierno de españa y otras deben estar en europa ese es nuestro planteamiento y no hemos recibido argumentos de peso por lo tanto para considerar razonable que se pida al gobierno de españa el traspaso de esa competencia o que se proponga

de esa competencia no somos favorables al dicho de que cuanto más autogobierno mejor depende de qué competencias y por lo tanto no votaríamos a favor de ese punto gracias

erantzun bat ematen dudan a la señora llanos verá no nos trate como ignorantes para que evitemos nosotros hacer también lo propio usted conoce cuál es la naturaleza del registrador mercantil o de la

es de acceso público cierto que para actuar en monopolio privado cobrando arancel sobre un servicio concreto diferente acceso público y función pública que cumpliría el funcionario que sin duda conoce y es que de cara a la seguridad social

o de autónomos o de trabajadores por cuenta propia es decir de empresarios

como parece que es la naturaleza que usted defiende nos dice que no tiene coste este servicio se tiene que ver financiado

o por parte de los registradores que es verdad que han mencionado este riesgo esta posibilidad o por parte de los ciudadanos lo que es imposible es que no tenga coste me da la impresión de que con su explicación

de hacer la ley no me siento reconfortado señora llanos con la victoria moral que vamos a obtener hoy porque como digo esto lo que dibuja

contra una imposición que se va nuevamente a perpetrar en madrid y por eso precisamente le digo que no me siento reconfortado no me parece una victoria moral porque nuevamente

visualizar a verificar esa circunstancia señor zorrilla y tal vez aprovechando para responderle al señor maneiro nosotros en este punto cuatro la forma que yo tengo de interpretarlo al menos no es una mera exigencia de competencia hago una lectura amplia para decir que ciertamente

solicitar que el registro civil se mantengan los parámetros actuales y para eso la única posibilidad que se me ocurre es que lo podamos gestionar desde aquí mismo espero la estrategia que me va a explicar el señor zorrilla pero le voy a decir cuál es el dibujo

sí o no no título de habilitación vía veinte barra dos mil once si o no respuesta no delegación graciosa sí o no

un planteamiento que hizo el partido nacionalista vasco sí o no resultado no

y que me suena más aún a un conejo recién sacado de la chistera es este el camino por el cual ustedes es decir retrotraerse a la situación anterior a la ley veinte barra dos mil doce

me dicen que reforma estatutaria tampoco cuando ustedes proponen que se traslade al grupo a la ponencia de autogobierno

perspectiva de que se pueda llevar esto a la práctica pero tal vez más que hablarme esa

de la visión que ustedes tienen de la ponencia de autogobierno creo que

la sensación que tengo es que no se le da ningún futuro a una cuestión que tiene fecha de caducidad y que ustedes saben que es el quince de julio le digo que espero que me explique

y espero que me explique cuáles son los pasos que están ustedes dispuestos a dar ahora si lo que me viene a explicar es la relación de todas esas circunstancias en las que ya se le ha interpelado al

el esfuerzo que ustedes realizan yo no les niego tesón al consejero diez de junio de dos mil trece reunión con gallardón reiterado en el grupo de trabajo del cuatro de julio de dos mil trece mientras que el consejo de gobierno redactaba el real decreto de ley alegaciones presentadas ante el proyecto de ley

las asume también por parte del gobierno enmiendas planteadas por el grupo nacionalistas vascos en la tramitación de del decreto real en el congreso de madrid

sustancia por último en esa última reunión sectorial con el ministro parece que se le vuelve a trasladar el caso pero veo otra vez que no hay ningún tipo de eficacia y es que esa es la cuestión que no niego

eficacia voy a terminar haciéndome una pequeña autoenmienda en el punto tres porque es cierto que solicitamos que el empleo público de la desaparición ya llegando

intentando recolocar a esas personas tal vez en la nueva oficina jurídica o en otros puestos es una forma de perder empleo público es decir

que podrían haber surgido y de esta manera no van a surgir es precisamente esta la situación en la que nos encontramos que yo creo que es de una gravedad suficiente

que nosotros estuvimos presentes y que quedó muy claro y no hay otra explicación

porque el señor consejero nos merece toda la credibilidad y los datos que ahí expuso se constatan con hechos e hilando con esto usted decía que

recuerdo lo que decía el veinte de febrero del dos mil catorce decía luego noticias y rumores señora gallastegui hay algunas como la última que aparecía y que daba por hecho que iban a ser los registradores de la propiedad los que lo llevaran fueron negados por el propio ministerio instantáneamente pero da igual que usted le diga una cosa

dicen que tenemos que tener mucho cuidado con esa credibilidad

a eh bildu que decía de dar pasos bueno yo no voy a repetir le iba a repetir

cuál ha sido el planteamiento del gobierno y ese tesón demostrado con hechos esa propuesta escrita al ministerio

no lo voy a repetir y usted dice que lo que quiere son hechos hechos digamos constatados de que

eh bildu nos diga cómo si tiene una varita mágica que puede conseguir cómo título habilitante cuál el del real decreto veinte barra dos mil once ya hemos dicho

es evidente que sería inconstitucional cuáles son los alternativas el no ya lo sabemos nos lo dice el ministerio no hace falta que nos lo digan ustedes pero digan cómo igual tienen

esa capacidad de conseguir alguna fórmula que permita que el registro civil siga funcionando como hasta ahora en esa comisión de veintinueve de octubre y en esa búsqueda de la estrategia que demandaba el señor arzuaga

recurso de inconstitucionalidad que ustedes eh bildu demandaron al tribunal constitucional español

y ya les dejó bien claro el consejero que es una vía que no merece la pena explorar por qué porque el real decreto ley ha sido ratificado posteriormente como ley con lo cual el supuesto habilitante el presupuesto fáctico habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad queda salvado jurídicamente y por el otro lado en cuanto a la materia lo mismo y hay un hecho evidente en

registro civil y cataluña no ha presentado recurso de inconstitucionalidad nosotros lo vamos a presentar sin ser competentes en esa materia habló también de un frente común con otras comunidades autónomas contra el gobierno español

ya le dijo el señor consejero que hay un dato importante a tener en cuenta

del estado español donde muchas de esas comunidades autónomas

por el partido popular con lo cual como alternativa vale pero como resultado

en su empeño en querer la asunción de las competencias ejecutivas aunque se ha puesto en manifiesto que no van a servir para nada seguían insistiendo en esa asunción de las competencias

reforma estatutaria yo no sé si eh bildu está a favor de hacer una reforma estatutaria para incluir para solicitar

me gustaría que nos lo hubiera dicho no he tenido tiempo en la primera ocasión de preguntárselo pero bueno

no es para este tema en concreto no es para este tema en concreto y nuestra visión creo que antes se la he anticipado en esta materia

hubiera un sistema judicial vasco creo que ahí podemos hasta compartirlo entonces

nosotros hemos metido esa cuestión dado que se está trabajando en una ponencia de autogobierno en el que

la vigencia y la actualidad del estatuto en vías de llegar a un nuevo estatus político si tan importante es para ustedes vamos a trabajar ahí que es donde tiene cabida

respecto a la ley graciosa o no graciosa ley orgánica no graciosa pues sinceramente creo que también es perder el tiempo por lo tanto seguimos insistiendo en que la mejor estrategia lo realmente eficaz

esta es la mejor manera de retener las funciones que actualmente mantenemos sobre el registro civil y esto es compatible

a modificarse por tanto no nos queremos retrotraer a no sé qué

donde entendíamos y entendemos que se desjudicializaba el registro civil pero dentro del ámbito judicial finalmente y termino

dentro del ámbito judicial de la administración de justicia no llevado por registradores de la propiedad y mercantil y en el caso de que termine implantándose el modelo propuesto

del empleo público es importante crear empleo pero más importante es mantener el existente y también en la línea que decía

esa intranquilidad incertidumbre que se está generando en ese personal con las repercusiones negativas que puede tener en el sistema de justicia dado que hemos llegado a una transaccional

porque no ha sido completa con la proponente en los tres primeros puntos solicitaríamos la votación por puntos

aclarar que en ese punto cuatro votaremos en contra pero por distintos motivos de los expresados

gracias señora presidenta señora gallastegui si por debatir yo puedo debatir de cualquier cosa sea

lo que aquí se decida ejecutivo porque corresponde a otra cámara como en este caso es el congreso de los diputados si podemos también debatir que no haya guerras en el mundo que vamos

lo que ocurre es que efectividad real más allá como le decía de la victoria moral

del congreso de los diputados de lo que no se gana allí donde realmente tiene efectividad se gana aquí vía victoria moral pues si para usted le vale

con lo cual si se queda contenta yo encantada pero ahora efectividad la que tiene la verdad y usted habla de soberbia

cuando se debatía esta ley en diciembre en el dos mil catorce mostrando la voluntad

él comentaba es que se había encontrado un proyecto de ley y para que la vacatio legis no fuera más allá del dos mil quince para terminar de perfilar

era mejor continuar la tramitación y a través de eso llevar a cabo a través de un proceso como digo de diálogo de modificaciones y ajustes mejorarlo y habla de fines espurios

fuese que los registradores mercantiles van a tener la bicoca llevando el registro civil hubieran estado encantados y los primeros que pusieron sus reparos fueron ellos cuando era un rumor porque lo que se daba por cierto era una cosa que todavía

con varias instituciones también con los secretarios judiciales entonces era un rumor y se daba por hecho y se daba por hecho finalmente se ha decidido que sean que ya digo si fuera

con las orejas como se suele decir vulgarmente y no es así o sea que los fines espurios pues

lo de funcionarios públicos señora gallastegui lo he subrayado en fosforito porque como me llamó tanto la atención lo pone usted aquí

pero usted lo pone usted lo pone y el carácter claro también estamos nosotros de acuerdo con un registro civil público accesible y gratuito pero es lo que pone en la ley es que es lo que viene en la ley

los trabajadores trabajan gratis la infraestructura se mantiene gratis no tiene un costo no tiene un costo es que cualquier diría que es que ahora lo que se tiene en este momento

absolutamente gratuito la verdad es que la enmienda

eso rechazarlo lo que no se consigue rechazar allí que se rechace aquí

porque la ley de dos mil once decía que no se podía seguir la llevanza del registro tendría que cambiar y tenía que salir

porque los órganos judiciales se tenían que dedicar a lo que es su función que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado esto no es una auto enmienda porque si se mantienen igual es que se mantienen igual y eso es precisamente lo que la ley del dos mil once decía que no se podía mantener igual

con relación al mantenimiento del empleo yo no le he hablado de un acuerdo yo le he dicho que se ha sentado a hablar con los sindicatos en noviembre en noviembre se sentó a hablar en la mesa y entre otros puntos uno de los que se trató fue el del registro civil y después en declaraciones ha dicho que también se ha mantenido en contacto so lo dirá el señor erkoreka si es verdad o no con aquellas comunidades autónomas que tiene el personal para

se pueda mantener ese compromiso del mantenimiento del empleo público y se ha comprometido y lo de carácter gratuito y público viene en la ley y con relación a la imposición pues oiga mire esto y si es que se lo ha dicho el propio partido nacionalista vasco esto

no es una imposición es el entramado institucional y constitucional que tenemos nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea